duen jarrera eredugarriarekin eta bete behar duen giza funtzioarekin volvemos a hablar de las obras públicas

y por qué no sí también de obras privadas financiadas con dinero público

en el dos mil siete se habló de esta cuestión durante el debate una proposición no de ley formulada por los grupos parlamentarios nacionalistas vascos eusko alkartasuna y el grupo mixto ezker batua berdeak en aquella sesión

en los procedimientos de contratación como resultado de aquel debate se aprobó una instrucción al consejo de gobierno

seis barra dos mil ocho de incorporación de cláusulas sociales en el año dos mil once también se trajo

sobre el cumplimiento del convenio territorial pertinente en las obras públicas a pesar de que se aprobó por unanimidad tampoco se está cumpliendo lo que en aquella proposición no de ley se solicitaba actualmente este tema

y hoy mismo esta misma mañana se ha repetido el sujeto de esta proposición no de ley y aún seguimos sin entender muy bien

a pesar de todos estos debates de las conclusiones de los mismos de las decisiones tomadas

no ha sido suficiente para que se apliquen los criterios sociales y para que se cumplan las condiciones de trabajo de los convenios provinciales hala ere

la administración debe garantizar que en todas las contrataciones de obras públicas se cumplan las condiciones establecidas en el convenio del sector de la provincia

los convenios porque a pesar de que en algunos pliegos de condiciones aparezca expresamente la obligación de que la empresa contratada deberá cumplir el convenio provincial

cumpliendo de hecho no tenemos herramientas por lo visto para que se cumplan las condiciones que se establecen como hemos dicho esta mañana en el caso de las obras de san mamés el convenio de construcción

o para hacer que se cumpla en ese aspecto la administración

horregatik tresnak behar ditugu hau bermatzeko los propios sindicatos han denunciado en numerosas ocasiones que no cuentan con los suficientes mecanismos para poder

y ese es uno de los motivos por lo que proponemos elabore una ley también porque será el mejor instrumento para que cualquier sindicato pueda denunciar una situación irregular ante cualquier juzgado

se ha preguntado a dos de los consejeros del gobierno sobre la aplicación del convenio colectivo provincial de la construcción en diferentes obras yo misma le pregunté primero al señor erkoreka sobre las obras de san mamés y la

sobre este mismo asunto ambos mostraron su preocupación

unas condiciones dignas en todas las obras y es más el señor aburto terminaba su intervención solicitando a nuestro grupo que pasemos de las palabras a los hechos y lo mismo

hoy si realmente tienen interés y voluntad den un paso más un paso de gigante para dotar a toda la administración vasca del mecanismo

y que se aplica el convenio del territorio en todas sus obras actualmente contamos con diferentes directivas europeas normativas

que recomiendan la incorporación de cláusulas sociales en los diferentes pliegos de condiciones sin embargo tal y como han venido denunciando los diferentes sindicatos

por lo tanto la palabrería y las buenas intenciones no garantizan su cumplimiento y es por eso que mediante esta iniciativa solicitamos que se dé un paseo y que se traiga a esta cámara

en nuestra proposición de ley planteamos que en dicha ley se regulen diferentes aspectos lehena azpikontratazio guztiak

oscar la cadena de subcontrataciones que hay en muchas de las obras

en el contrato original es primordial que se establezcan las mismas obligaciones para todas las empresas que intervengan en la ejecución de la obra

lo que antes era ilegal no aplicar el convenio correspondiente pasa a ser legal y una ley será sin duda el mejor instrumento para blindar los contratos que realizan en la administración pública vasca

hemos registrado una proposición no de ley en relación a esto tras lo ocurrido la problemática que están sufriendo las trabajadoras

ekonomikoak azken horiek neurri handi batean arazoaren jatorria baitira y me quiero detener especialmente en este punto durante décadas a la hora de conceder una obra pública a una empresa

en ocasiones técnicos y en muy pocas si acaso de forma muy ocasional los criterios sociales y esta tendencia la tenemos que cambiar

es clave es clave porque muchas de las empresas que se presentan a los concursos públicos para ser más competitivas en este sentido es decir en el sentido puramente económico tratan de reducir sus costes laborales para obtener el contrato en cuestión

no invirtiendo en tecnología para que mejore la productividad tampoco creo que la respuesta es clara y ustedes igual que nosotros

salariales que se resume en reducción de salarios y o en aumento de las jornadas en definitiva

y con el aumento de la precariedad también como ya hemos denunciado en numerosas ocasiones el aumento de la siniestralidad laboral sei

proposatzen dugu eta horrexegatik zortzi hilabeteko epea eskatzen dugu por lo tanto por todo lo comentado espero que el resto de los grupos recapaciten sobre su intención de voto y den el voto favorable a nuestra proposición no de ley besterik gabe eskerrik asko

buenas tardes gracias presidenta bien la propuesta que trae bildu en este punto

tiene por objeto instar al gobierno a que traiga un proyecto de ley para garantizar el cumplimiento de los convenios colectivos

y en la contratación pública entiendo de todo el sector público vasco la propuesta entendemos que tiene por objeto

ámbitos institucionales porque realmente sobre la

y sobre el hecho de que en la obra pública como mínimo

promueven los poderes públicos se tiene que cumplir con los convenios colectivos pues ha dado lugar como ha dicho

a varios pronunciamientos pero se ve que a día de hoy seguimos hablando de lo mismo sin que esto tenga garantía y bildu nos propone

con dificultad entre otras cosas porque la competencia para legislar en materia de contratación pública la legislación básica es competencia del estado

no quiere decir que la comunidad autónoma no tenga competencia tiene competencia de desarrollo legislativo pero no para tema de la ley en este sentido

la inclusión de cláusulas sociales en esta ley

y hemos tenido varios pronunciamientos que ya se han referido en dos mil once resoluciones del dos mil ocho la enmienda de partido nacionalista también recuerda que el gobierno de patxi lópez hizo una resolución planteando estas exigencias pero

se siguen observando incumplimientos en materia de derechos laborales de convenios en la realización de obras y esta mañana

con relación a san mamés por lo tanto desde la política y desde tiempo atrás se ha intentado de alguna manera en este ámbito vasco efectivamente de que esto quedara

y que por lo tanto este propósito general no ha llegado a materializarse del todo por lo tanto los socialistas creemos que efectivamente un tratamiento normativo no esta mal pero como digo no tenemos esa competencia para legislar en materia de contratación pública en principio

que el gobierno vasco elabore un pliego de cláusulas administrativas generales por qué

los pliegos de cláusulas administrativas generales que operan en el estado son pliegos del año mil novecientos setenta

en el artículo ciento catorce habilita a las comunidades autónomas a que puedan elaborar sus propias pliegos de cláusulas generales alguien dirá pero bueno

sí pero lo que nosotros proponemos aquí es la elaboración de cláusulas generales por qué porque las cláusulas generales tienen fuerza normativa no fuerza contractual es importante porque en el contrato obliga a las partes pero es que la fuerza normativa

es lo que en ese ámbito de la comunidad autónoma vasca en el caso de que se llegara

tendría lugar el pliego de cláusulas administrativas generales

no contractual y como dice el artículo sesenta y seis del reglamento

contendrán las declaraciones económicas jurídicas y administrativas que el gobierno autonómico en este caso decida claro no se menciona cláusulas sociales pero es que lo social está insisto en lo administrativo en lo jurídico en lo económico en lo político está en todo

lo que hacemos es plantear que el gobierno vasco con esa habilitación legal realice un pliego de cláusulas generales entre otras cosas que además podría servir para que el gobierno vasco incluyera allí todas aquellas cuestiones que consideren ateniente a la contratación pública en todo el sector público vasco

una cláusula que dijera que efectivamente los adjudicatarios los subcontratistas de obra pública suministro o servicio porque esto no podemos

en relación a toda la contratación pública pues que efectivamente

que dé lugar al órgano de contratación a resolver el contrato

y blinda y garantiza el cumplimiento de los convenios esté en conocimiento de todo aquel que decida licitar a un concurso

cualquier institución de manera que la redacción de un pliego de cláusulas generales

los proponentes entra dentro de nuestro hacerlo competencial y por lo tanto podría materializarse

que como digo se han visto que no han terminado por ser del todo eficaces pero en cambio este instrumento que es normativo no se ha aplicado

esa facultad de poder hacerlo y pensamos que eso daría garantía además

tenemos tendencia a verlo siempre desde la perspectiva del derecho de los trabajadores naturalmente que sí pero es que hay otra vertiente

importante es que las empresas locales cómo pueden concurrir

si tienen que ir con los costes laborales que tienen que aplicar en los convenios vigentes y cómo pueden competir con empresas que procedentes de otros lugares no tienen esos convenios y tienen unos costes laborales más bajos

poco leal y por lo tanto plantear que el cumplimiento de los convenios sea condición indispensable para poder

y que el no cumplimiento faculta el órgano de contratación a resolver el contrato con un

que sería lo que daría finalmente esa garantía a todo contrato público de cualquier institución sea cual sea el nivel de la administración que salga en el ámbito vasco

creemos que por su propia naturaleza por la habilitación legal que nos da la ley de contratos permitiría efectivamente fijar de forma diáfana y clara que este es un elemento fundamental de la contratación pública

pero creemos que tiene un fallo de fundamento que es

que la metodología planteada sería recurrida rápidamente dejándolas sin efecto esta fórmula que planteamos creemos que tiene la misma eficacia

a las mismas garantías que se están persiguiendo y no estaría adoleciendo o aquejada

una ley que contuviera ese tipo de cosas porque no tenemos esa competencia por lo tanto la obligatoriedad de los pliegos de condiciones administrativas generales que tienen un carácter ex lege ex contractus inciden sobre el carácter vinculante

para toda constatación en definitiva esta es la propuesta que hacemos

los representantes de los grupos sin haber alcanzado ningún acuerdo básicamente entiendo que este es un debate donde cada cual

que seguramente todos compartimos aquí y esta es la nuestra esta es la que nosotros hacemos esperando que encuentre acogida en los respectivos grupos nada más y muchas gracias pidiendo

sí gracias presidenta buenas tardes de manera muy breve para remitirme al debate de la mañana y a lo que en ese debate de la mañana nosotros hemos

el tercer punto del orden del día y en relación a una moción planteada por upyd por lo tanto me remito

dos de los puntos ya aprobados en el debate de la mañana y que incorpora un tercero un tercer punto pactado en su momento por el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi y que fue aprobado también en esta cámara si no recuerdo mal en el mes de julio en la diputación permanente también

se valore positivamente el hecho de que las condiciones laborales del personal de las empresas concurrentes estén reguladas

de un convenio colectivo por lo tanto esta será la enmienda que nosotros votaremos en relación a la propuesta de eh bildu entendemos que plantea un imposible plantea un proyecto de ley cuando no tenemos esa competencia y además incorpora

que nosotros consideramos políticamente inaceptables como la inclusión de criterios lingüísticos o incluso claramente ilegales como la propuesta de no realizar contratos con empresas que apliquen la reforma laboral por esta razón votaremos en contra de la iniciativa original votaremos a favor de nuestra enmienda y en todo caso hemos escuchado los argumentos del grupo socialista escucharemos atentamente los argumentos del grupo nacionalistas vascos por si fuera posible que

gehiago luzatuko horretan vamos a votar

porque el contenido de las cláusulas sociales que se recogen en las instrucciones de contratación de dos mil ocho y dos mil nueve

de lo que nos propone eh bildu en su iniciativa

mientras que las instrucciones aprobadas por el gobierno se refieren a todo tipo de contratos sean contratos de obra sean de suministro o sean de servicios la verdad es que no entendemos por qué dejan de lado los contratos de servicios en esta iniciativa por ejemplo los contratos de limpieza

les preguntaríamos si acaso no les importa las condiciones de trabajo de las personas que trabajan en ese sector que mayoritariamente y por lo que yo conozco

de trabajo y por eso las cláusulas sociales se aplican de contratos también en estos además en su proposición no de ley identifico varios errores únicamente nos vamos a detener a comentar dos la primera consideración sería que

un contrato no es una ley sino que es un pliego de cláusulas administrativas particulares en nuestra opinión señor itxaso y el segundo

diríamos que el régimen de infracciones y sanciones en materia laboral incluida la prevención de riesgos laborales tiene su ámbito específico en la legislación laboral me va a permitir que le diga a la señora que tengo la sensación de que a través de esta iniciativa porque además se lo han mencionado en el discurso nos ha venido a vender

foral aprobada por la diputación foral de gipuzkoa y yo le tengo que decir que he analizado también esa norma foral y le tengo que decir que

allá por el dos mil ocho que por cierto no nos las queremos arrogar porque precisamente era consejero de justicia y empleo una persona de eusko alkartasuna porque como ya he indicado con anterioridad

a todo tipo de contratos no solo a las obras y porque bildu

con su afán de proteger a los trabajadorescon esta norma foral igual lo que consigue es el efecto contrario y voy a intentar poner un ejemplo

que por ejemplo va a trabajar a la durango beasain y que en el convenio de bizkaia o en el de su propia empresa

de gipuzkoa se le está protegiendo pues nosotros entendemos que no la publicación de esta

respetando los convenios en las obras de la diputación foral de gipuzkoa pues evidentemente que no y hay distintas denuncias en este respecto por ejemplo

ha denunciado que en esta obra se han conculcado los derechos de los trabajadores

trabajando muchos sábados domingos incluso festivos así como que el salario percibido estaba muy por debajo

y también hemos tenido conocimiento de las condiciones a las que están sometidos los trabajadores del corredor durango beasain

accidente mortal con denuncias de los sindicatos por los ritmos de trabajo alarmantes la presión constante además de las denuncias por la falta de seguridad debido al mal estado de la maquinaria y otro

los posibles problemas de legalidad que pueda tener la referida foral y es que la contratación pública en la unión europea es una política de mercado interior por lo tanto estamos sujetos a principios de obligado cumplimiento como son la libre circulación de mercancías de personas

y hay una sentencia sentencia del tribunal de justicia de las comunidades europeas que es el caso rüffer y que nos viene a decir que es contrario al derecho comunitario

adjudicadora designar como adjudicatarios de contratos públicos a las empresas que cumplen con la cláusula que nos ocupa y por otra parte también les quiero comunicar que he tenido conocimiento de que la autoridad vasca de la competencia ha interpuesto un recurso en la jurisdicción contenciosa administrativa

foral de gipuzkoa por entender que hay disposiciones que restringen

pública en gipuzkoa y lo troncal radica en que la inclusión en los pliegos como imperativo de exigencia imperativa el convenio de gipuzkoa puede cercenar el derecho a la libre competencia

hasta ahora hemos presentado nuestra enmienda que será evidentemente la que votemos por las razones que hemos dicho porque entendemos que es más ambiciosa

de contratación del gobierno besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

gracias señora presidenta buenas tardes a todos bien yo

probablemente se han dicho ya aquí pero sí quería hacer una primera mención que es la de que yo creo que en la propuesta de bildu

se vienen a combinar dos aspectos y por eso yo creo que está bien hecho el que la vayamos a debatir de forma separada a la de la mañana

y esa ley que pretende ser la panacea que solucione todos los males sobre la actuación de la

a propósito de la moción presentada por upyd y de hecho la enmienda como bien ha dicho el señor maneiro que él ha presentado es parte de su iniciativa y

laborales territoriales en obra pública es reiterado como he dicho aquí en octubre y sí en una propuesta de ea no le quieran quitar al señor agirrezabala la autoría de esa iniciativa

que es verdad que venía a reiterar en gran parte esa iniciativa referida a la contratación de la administración cuando ejecuta obras públicas aunque en esa de ea pretendía ir más allá y pretendía abarcar todo el sector de la construcción pues bien en ella

la necesidad de cumplir las disposiciones del convenio laboral de aplicación en el territorio

y también a que se valorase en esos pliegos de las empresas o utes

el convenio y en un segundo punto se instaba que se estableciese un sistema para comprobar qué jornadas y retribuciones salariales de las personas que trabajasen en esas obras públicas se correspondiesen con las prescritas en los convenios de permitiendo a su vez que las centrales sindicales con representación en la mesa negociadora pudieran tener acceso a esa documentación para confirmar de esa manera la aplicación del convenio por lo tanto podemos comprobar como hemos dicho a la mañana que en ese pleno se debatió que se instó al gobierno vasco

para garantizar el cumplimiento de los convenios laborales en materia de obra pública en ese pleno se llegó a un acuerdo por unanimidad en el que

por dos motivos fundamentales una porque el mandato era claro y unánime y segundo porque creemos que era lo que se podía exigir desde esta cámara gobierno ese cumplimiento exhaustivo de los convenios laborales en lo relativo a todas las condiciones de trabajo tanto en cuando contrate directamente

subcontrataciones y se debe primar aquellas que no hayan tenido sanciones y establecer mecanismos de control para que se cumplan estas prescripciones

porque era necesario que se adoptasen esas medidas de inspección para garantizar el cumplimiento de los convenios de trabajo y más allá de las obras públicas porque como digo ese acuerdo de octubre

más allá de las obras públicas el que debe vigilar es la inspección laboral tal y como hemos dicho esta mañana

solicita que se traiga una ley a esta cámara en el que se incorporen

y luego se piden otra serie de contenidos con relación a las cláusulas sociales ya le hemos dicho aquí nosotros estamos a favor de las cláusulas sociales en la contratación pública porque pueden ser un instrumento al servicio de los poderes públicos para poder cumplir los fines

públicas es decir la contratación puede y debe ser una técnica que permita conseguir objetivos sociales ambientales o de investigación y en ese sentido las cláusulas sociales constituyen la inclusión de estos aspectos concretos de política social o sostenibilidad ambiental en los procesos de contratación pública

que prevé mecanismos para la introducción en la contratación pública de este tipo de cláusulas así por ejemplo se puede fomentar el empleo para personas en situación o riesgo de exclusión social para facilitar su incorporación al mercado sociolaboral

porque permiten como decía aprovechar el potencial que la contratación pública tiene pero para ello no es necesaria la elaboración de una ley

la señora otadui el órgano de contratación correspondiente puede introducir esas cláusulas sociales dentro del marco que las normas de contratación pública permiten el gobierno vasco

tiene instrumentos como la resolución seis barra dos mil ocho que fue desarrollada por el acuerdo seis de octubre de dos mil nueve que permiten hacerlo

introducir y yo como ya se me ha achacado esta mañana que no sé me va a reconocer ninguna postura buenista pues haciendo

voy a ser bastante menos educada no sé

en el uso de la palabra y le voy a decir que la iniciativa que usted propone aquí es un despropósito un canto a la incoherencia y a la contradicción porque se solicita primero la elaboración de una ley y se dice previamente qué contenido debe tener además se solicita la elaboración de una ley sin tener las competencias en muchos de los aspectos para regularlas pero es que además

que me puede parecer hasta normal pero por otro

incluir prescripciones no legales como excluir de la contratación a empresas que apliquen la reforma laboral es decir que se hace un llamamiento público para que esta cámara

otra ley es decir la reforma laboral y la reforma laboral puede gustar o no

vigente y a nadie se le puede excluir por cumplir la ley nos parece inaudito que lo que pretendan sea legislar contra la propia legislación y que se pidan sanciones para aquellos que no cumplan la ley y luego lo que estén proponiendo sea una iniciativa es precisamente incumplir la ley en cualquier caso

y la falta de seriedad a la hora de plantear propuestas debe tener ciertos límites no se pueden presentar determinadas iniciativas a sabiendas de que no se van a ejecutar en los términos reclamados

no sabemos si siempre aplica las mismas recetas se afirma también en otro de los puntos que se debe disminuir el peso de la oferta económica como criterio de adjudicación pero no podemos hacer abstracción de que desde la administración se debe buscar en la medida de lo posible el ahorro económico y la eficiencia de la administración de los recursos públicos

y las condiciones laborales de todos los trabajadores la legislación actual recoge ese supuesto a través del concepto de oferta económica más ventajosa

pretende imponer la obligatoriedad de unos criterios lingüísticos en las cláusulas de los pliegos

de ustedes somos perfectamente conscientes de lo que eso conlleva conlleva a posturas maximolistas y a generar conflictos y enfrentamientos lingüísticos por todo ello y creo ya le habrá quedado suficientemente claro este grupo va a votar en contra de esta iniciativa fundamentalmente un canto a la incoherencia como le he dicho porque la incoherencia se da en el título con el contenido en el propio contenido se quiere usted o pone como excusa el cumplimiento del convenio laboral para pretender

itxaso usted ha hablado de competencias y de que no tenemos competencias para legislar sobre esta ley

y si en este parlamento se hacen leyes tendremos competencia también para desarrollar esta ley y si no la tenemos o invadimos alguna otra competencia no vamos a ser nosotros los jueces o el tribunal

ya se encargaran otros tribunales de decir o no si tenemos competencia

y repito en gipuzkoa se ha hecho se han dado pasos en este sentido con los votos favorables de su grupo por lo tanto

si hay voluntad se puede hacer además usted mismo

a este parlamento un proyecto de ley exactamente el proyecto de ley de vivienda

y es un tema que también está recurrido por el tribunal constitucional por lo tanto que hablemos de competencias de si tenemos competencias o no

que no puede ser el impedimento para votar a favor de esta proposición no de ley y usted mismo ha dicho que suscribe el espíritu y que compartimos

a la señora otadui no sé si a la primera intervención

o no me han entendido pero cuando hablan ustedes de la resolución de que efectivamente hay una resolución sobre el tema de las cláusulas sociales les hemos dicho que es que no se están cumpliendo que está muy bien que haya esa resolución

si con esa medida no conseguimos que se cumplan estas condiciones no sirve de nada y le voy a poner ejemplos

el departamento de empleo y asuntos sociales da cierta información respecto a esta resolución

director de servicios comunica que no ha realizado ningún contrato con dichas entidades en el año dos mil ocho respecto a la reservas de contrato de centros especiales de empleo de personas con discapacidades a empresas de inserción social o laboral

en cultura en el dos mil nueve no ha realizado ningún

en interior no ha realizado ningún contrato reservado solicitando ampliación de información sobre empresas de inserción y centros especiales de empleo y sus campos de negocio

por medio de su directora de servicios también comunica que durante el año dos mil nueve no se ha realizado ningún contrato reservado a empresas de inserción los demás departamentos no envían respuesta al requerimiento

dice en relación a la contratación verde después de tres años del acuerdo de gobierno sobre incorporación de criterios sociales ambientales y otras políticas públicas en la contratación de la administración de la comunidad autónoma vasca y de su sector público

incluidos en el ámbito de actuación de este el nivel de incumplimiento sigue bajo y no presenta importantes evoluciones sino que parece bastante

tengo más muchos más de emakunde de muchos más pero bueno no quiero agotar mi

todos los ejemplos por lo tanto si en matemáticas cero por cero es cero en política nada por nada es nada

va a haber ninguna irregularidad en las condiciones o en las diferentes obras públicas somos conscientes de ello ya lo sabemos pero por lo menos es una herramienta es un instrumento más

y digo que es una herramienta un instrumento más que los

y que hay que seguir el camino de gipuzkoa pero es que no lo digo yo solamente no lo dice eh bildu los diferentes sindicatos así lo vienen reclamando

venía en la prensa publicado que la diputación de gipuzkoa ha tomado una medida más una herramienta poniendo un número de teléfono para que cualquier trabajador de sus obras públicas pueda denunciar cualquier

y es que cuando hablo de los sindicatos no solamente me refiero a ela y lab también txema herrero de comisiones obreras señala que la diputación de gipuzkoa da un paso más en la dirección de no mirar para otro lado e insta a las diputaciones de bizkaia y de álava a adoptar acuerdos como el alcanzado en gipuzkoa

y bueno no me quiero alargar en exceso pero vuelvo a solicitar

no había analizado que efectivamente los pliegos de cláusulas generales que

pero también es verdad que cuanto más se avancen las cosas no solo se aprende más sino que también puede aumentar la confusión aquí estamos todos de acuerdo en el hecho nuclear contratación pública

cúmplanse cúmplanse los derechos laborales los convenios de aplicación

que por lo que nos ha dicho la portavoz del partido nacionalista podría no ser esto una pretensión acorde al ordenamiento ha comentado la sentencia

entonces en ese sentido qué es lo que pasa si nos amenazan los tribunales de la competencia igual lo que estamos hablando no tiene sentido

porque es verdad que todo esto es complejo y para mí mucho más y en cinco minutos ni cuento pero hay una cosa que es segura y a mí me gustaría exponer esto dado que son obras lo que ha traído

el proyecto tiene una sistemática presupuestaria se divide por capítulos por partidas y por unidades de obra a la hora de fijar los costes

qué costes se tienen en cuenta los materiales los costes energéticos y los costes laborales pero qué costes laborales los costes laborales del lugar

no los costes laborales de allende el océano los del lugar y por lo tanto los adjudicatarios tienen que ser conscientes que cualquier reducción sobre el precio tiene que gravitar sobre su optimización

sobre su rendimiento sobre su organización pero no puede ser sobre unos costes laborales

por lo tanto yo creo que la competencia tiene muchos que decir pero cuando realmente se vulneran normas de competencia pero esto no son

son los que son y son los que se fijan y las reducciones se tienen que hacer desde el punto de vista de la optimización del trabajo sobre la base de quitar a los trabajadores lo que de principio se ha tenido en cuenta por eso nosotros no podemos suscribir la enmienda que plantea el partido nacionalista porque también es bienintencionada pero claro cuando bildu trae aquí una propuesta o cualquier otro grupo el grupo socialista entiende que tiene que tratar de ver qué aporta de nuevo al statu quo es decir a la situación que está

dejado claro es una situación en la que todos estamos de acuerdo que se tienen que aplicar los convenios en la contratación pública lo reiteramos sucesivamente pero parece ser que esto no está del todo garantizado nosotros hemos hecho una propuesta que creemos que es viable que es

que competencialmente es asumible y hasta ahí pero su propuesta señora otadui es muy pacífica

y no aporta nada entonces bien es decir hasta ahora las cosas están como están y claro que las prescripciones particulares son obligaciones en el contrato pero lo que nosotros planteamos es que qué ocurre si una institución una sociedad pública una mancomunidad no incluye en sus condiciones particulares esta mención

y si alguna institución o algún órgano de contratación quiere hacer unas condiciones particulares que van contra las

eso tiene que ser previamente informado en este caso por la junta asesora de contratación administrativa es decir que ningún órgano de contratación puede poner las condiciones particulares que quiera si contravienen las generales y por eso entendemos que es una propuesta yo le digo a bildu que

le diré que lo constitucional en principio no es algo determinado cuyos confines son conocidos es algo interpretable es decir y la visión constitucional que hay entre unos grupos y otros grupos políticos es muy diferente

pero compartimos el espíritu de que eso tenga algún blindaje alguna garantía por eso hacemos esta propuesta pero no es para llevar la contraria

la finalidad última pero creemos que de los instrumentos posibles uno que aporta algo nuevo al estado de cosas actual es lo que

pueda contar con los apoyos necesarios nada más y muchas gracias eskerrik asko

me llama la atención que un parlamentario socialista no defienda la actuación del gobierno

si ustedes lo tenían tan claro por qué no lo hicieron en su día

bien no nos hemos puesto de acuerdo en la interpretación del artículo sesenta y seis

de recoger los criterios sociales es en las cláusulas particulares y ahí no nos hemos podido poner de acuerdo eta zulaika

que no se están cumpliendo le volvería a preguntar dónde no se están cumpliendo en san mamés berria en la durango beasain me ha intentado poner un montón de ejemplos

le he puesto ejemplos de que efectivamente se está cumpliendo con las instrucciones de contratación

como está convirtiéndose a ser habitual en la doble vara de medir que tiene

nos vienen a exigir a nosotros algo que ustedes no están cumpliendo en gipuzkoa porque la diputación

pero luego no se están ejerciendo esas labores de seguimiento y de control de que efectivamente se esté cumpliendo

foral y viene el diputado general de gipuzkoa y con sus declaraciones nos lo confirma

que si ela tenía conocimiento de que se estaban produciendo incumplimientos en las obras del corredor durango beasain pues que ela lo tenía que haber denunciado entonces

esto me lleva a preguntarme a ver si la diputación de gipuzkoa no tiene sus técnicos

y sus inspecciones correspondientes porque en este caso la responsabilidad sería por omisión

sí que tenemos noticia de esa última ocurrencia del teléfono al que ha hecho referencia de la diputación foral de gipuzkoa

los ciudadanos se conviertan en policías y de paso la diputación foral de gipuzkoa que haga dejación de sus funciones

yo también le tengo que decir que he hecho un seguimiento de las

viene presentando y he constatado que pregunta por

una serie de preguntas relacionadas con este tema y yo tengo para mí que no es fruto de la casualidad sino que es de una doble vara de medir que se pregunten por todos los accidentes menos por los accidentes en los cuales ustedes puedan tener responsabilidades o que bildu pueda tener responsabilidades

repito que no es fruto de la casualidad sino como bien vengo diciendo en esta segunda intervención es fruto de esa doble vara de medir que tiene bildu que normalmente se queda con la parte

porque a lo manifestado por mí en mi primera intervención ni tan siquiera se ha contestado yo señor

con bildu no con usted sí pero claro usted ha dicho que la fórmula que ha presentado a través de su enmienda como es una fórmula que no se ha ensayado vamos a ver si ensayándola

los experimentos con gaseosa yo

a través de las cláusulas generales eso se pueda realizar yo comprendo su espíritu y el objetivo porque además el objetivo que usted pretende es el que se pretendía en el año dos mil once y el que seguimos

seguimos pidiendo todos y creo que le hemos pedido en esta mañana al gobierno le hemos dicho

vigile expresamente que se contrate aquellos que cumplen los convenios laborales y que se establezcan fórmulas

que en el dos mil once se hizo pero yo no sé si la fórmula por mucho que usted

en determinadas cosas como luego pueden traer consecuencias de recursos con un poco de cuidado

de verdad que la capacidad de sorpresa una cree que ya no la puede ya está superada pero llega aquí eh bildu pleno tras pleno y damos un paso más porque hombre decir vamos a legislar y luego ya veremos que alguien nos diga si tenemos competencia o no oiga

de verdad creo que la imagen que tenemos los políticos a veces viene por estas cosas porque no se puede pretender no se pueden plantear
mesedez isiltasuna no se pueden plantear cosas que se sabe que son

y vamos a legislar y luego ya veremos si tenemos competencia no oiga no
primero vamos a legislar sobre lo que tenemos competencia isiltasuna isiltasuna mesedez hombre yo comprendo que ustedes el cumplir las leyes no es algo

pero es que en democracia y en estado de derecho las cosas funcionan así cuando no gustan se cambian por los procedimientos legales se cambian pero lo que no se puede hacer es yo legislo sobre lo que quiera

no porque eso de verdad no es serio y da una muy mala imagen y es que al resto no me ha contestado porque no tiene contestación porque se lo he dicho en mi primera intervención su iniciativa

es un canto a la incoherencia no se puede pedir

pedir que se excluyan aquellas empresas que cumplen la ley mire no sé si es que tengo que traer aquí el diccionario de la real academia de la lengua y leerle lo que es la coherencia aquí hoy ha habido bastante esta mañana todo un tratado pero vamos de verdad en determinados asuntos yo creo

serios y luego claro no me ha contestado lo de la política lingüística

porque de verdad pretender también meter en los contratos de obra pública la política lingüística lo que va a traer es exclusiones injustificadas va a conllevar a multas

siempre el modelo impositivo en materia lingüística esa política del calzador

porque el euskera patrimonio de todos se consigue con consensos como todo no con imposiciones nada más muchas gracias eskerrik asko

porrot egin du estamos ante una oportunidad histórica

se cae a pedazos se cae a pedazos porque está inmerso en una crisis estructural la crisis del modelo de estado no es una consecuencia sino que forma parte del origen de esa crisis estructural en la que está el estado español en ese sentido

que haga mucho más por la independencia de euskal herria y cataluña porque cada semana hace miles y miles de independentistas vascas y catalanes

vascas y catalanas tenemos la oportunidad de dar inicio a una segunda transición una segunda transición en ese estado una transición democrática de verdad

el eje de esa transición necesariamente ha de ser el derecho a decidir para las naciones sin estado que viven dentro de él seamos audaces aprovechemos el momento

una cuña democrática para que la puerta que se está abriendo no se vuelva a cerrar en falso espainiar estatuak zentralizaziorako joera arriskutsua

gracias presidenta buenas tardes eh bildu no quiere felicitar a la sociedad catalana ustedes

quieren felicitar a los nacionalistas catalanes y a sus irresponsables dirigentes políticos que se han adentrado y promovido una vía que es

que aplaudamos la vía catalana y las irresponsabilidades del nacionalismo catalán ustedes quieren que felicitemos y que aplaudamos a quienes proponen romper la convivencia en cataluña fraccionar la sociedad catalana y romper el país

un disparate nosotros obviamente no vamos a hacerlo porque defendemos la legalidad vigente

y defendemos la democracia upyd sí felicitaría a muchos millónes de catalanes

la convivencia y la democracia a los millónes que se han opuesto y se siguen oponiendo al pensamiento único nacionalista y a las mentiras habituales

el nacionalismo vasco la vía catalana propone vulnerar la democracia y lo que propone eh bildu y la enmienda firmada con el partido nacionalista vasco es reconocer ese despropósito la vía catalana

la ruptura del país nosotros no tenemos ningún problema en que haya quien defienda la independencia pero debe hacerse a través de los procedimientos legales establecidos y con respeto a la legalidad vigente y con respeto a la constitución española

a una mayoría del parlamento español para modificar la constitución española y esa mayoría ni la tienen ni la van a tener en todo caso

del nacionalismo y en concreto las mentiras también del nacionalismo catalán los nacionalistas catalanes pretenden una tropelía y un hurto

propósito que es absolutamente antidemocrático

hurtarnos al resto de los ciudadanos españoles nuestro derecho a decidir

la estructura del estado al margen del resto de los españoles y esto es absolutamente un imposible pretenden robarnos pretenden

sobre la estructura del estado algo que debemos decidir entre todos entre todos los ciudadanos del estado los nacionalistas pretenden cambiar el sujeto de soberanía que reside en el conjunto de los ciudadanos españoles el futuro del país nos corresponde a todos no solo a una parte mejor que aplaudirles sus disparates antidemocráticos tenemos que desmontar la falacia del derecho a decidir que ustedes eh bildu el partido nacionalista vasco los independentistas en cataluña defienden porque es una falacia y una gran mentira el derecho a decidir que ellos proclaman es una falacia el censo electoral

la soberanía corresponde al conjunto de los ciudadanos hay que cumplir y hacer cumplir la legalidad vigente y la constitución española

el estado de derecho los nacionalistas catalanes por tanto parece ser que con el apoyo del partido nacionalista vasco y eh bildu pretenden un fraude legal y constitucional la constitución española

pero a través de los procedimientos establecidos en ella y la vía catalana saltárselos por esto la vía catalana es antidemocrática la vía catalana que ustedes apoyan que eh bildu pretende que aplaudamos pretende

pretende dinamitar el estado y convertir a los catalanes en extranjeros en el resto de españa algo que es absolutamente inaceptable

al discurso emocional o sentimental nosotros apelamos a la razón a la legalidad vigente y al estado de derecho el nacionalismo catalán y la vía catalana quieren distribuirnos en tribus el nacionalismo catalán

y eh bildu pretenden romper la convivencia y la democracia no vamos a aplaudir este disparate todo lo contrario vamos a oponernos firmemente a este disparate absolutamente antidemocrático nosotros los demócratas los que creemos en el estado de derecho debemos defender

que ellos pretenden vulnerar es decir la democracia el interés general la pluralidad el bien común la unidad los derechos ciudadanos la libertad de pensamiento el estado de derecho y la convivencia

no debería mirar para otro lado el gobierno de españa no debería mirar

nosotros ni miramos para otro lado ni aplaudimos ni felicitamos ningún disparate tampoco este por lo tanto el gobierno de españa lo que debería hacer

al gobierno de cataluña que no que lo que propone y pretende es vulnerar la democracia y un fraude legal y constitucional gracias

gracias presidenta señorías señor arraiz

este es uno de esos debates de ciencia ficción que tanto gusta a los nacionalistas de todos los colores uno de esos debates parecen de otro tiempo que nos hacen perder el tiempo y nos despistan de lo que realmente interesa a la gente y debiera interesarnos a los representantes políticos

pero es también un debate que sirve perfectamente para retratar

en este caso concreto a euskal herria bildu cuyo carácter de izquierdas permítame que le diga parece quedar muy en precario con esta iniciativa porque podíamos entender de ustedes una propuesta de solidaridad con los funcionarios públicos de cataluña que eso sí que no tienen capacidad de decidir sobre la seguridad de sus nóminas y que quedan en entredicho por medidas que adopta ese gobierno de la generalitat que con tanto ardor

podíamos entender también una propuesta de solidaridad con los desempleados de cataluña con los profesores con los sanitarios con cientos de catalanes despedidos

de rechazo del deterioro y privatización de los servicios públicos de cataluña o de afectados de la política de recortes impuesta a los catalanes por el gobierno de la derecha nacionalista con el que sus socios catalanes comparten mesa y mantel pero no

a que esa realidad no se conozca a silenciarla lo que cubre con un manto de populismo los verdaderos problemas que tiene la sociedad catalana

con ese fantasmagórico derecho a decidir la agresión a los derechos sociales de los ciudadanos de cataluña por parte de un gobierno que si ha sido pionero en algo es en poner en marcha las políticas de recorte más salvajes que se han puesto en toda españa un gobierno que elude sus responsabilidades porque quiere hacer creer a la gente que lo que le ocurre no es consecuencia

sino de que españa está expoliando a cataluña y lo está haciendo además con la complicidad de ese partido supuestamente también muy de izquierdas

a lo que parece a bildu aquí también le gusta mucho más ese modelo de inestabilidad permanente y precarización social

en torno a un modelo de bienestar y de mantenimiento de los derechos sociales que es el que estamos defendiendo y salvaguardando los socialistas en esta cámara y en cuestiones

el alma nacionalista de bildu tiende a prevalecer siempre sobre su corazón de izquierdas y eso señor arraiz acaba definiéndoles a ustedes

y ahí se apuntan inmediatamente porque frentes nacionales no son solo

también los hay aquí en otros sitios y casi todos acaban siendo reaccionarios en el fondo señor arraiz a ustedes lo que les pasa es que siguen amarrados

que hasta el presente ha estado en la base de todos los partidos nacionalistas en euskadi

y queda por ver si algún día ustedes deciden liberarse de ese fondo

y aspiran en serio a ser una alternativa real de progreso al pnv porque no hace falta que le recuerde que hoy por hoy los verdaderos dueños de la casa del padre están sentados en este lado del hemiciclo

pretende que el parlamento felicite a la sociedad catalana y a su parlamento por ese camino que han emprendido para hacer efectivo eso que ustedes llaman derecho a decidir

nos quiere hacer creer que todo esto se está haciendo desde el acuerdo de las fuerzas políticas catalanas

disgregación y desencuentro que estamos viendo en cataluña no creo que merezca muchas felicitaciones por nuestra parte o se cree de verdad que ese camino hacía el derecho a decidir

de las políticas en cataluña o se cree de verdad que lo que ni siquiera es capaz de unir ni a los nacionalistas catalanes en el gobierno es un factor de unión de la sociedad catalana se cree de verdad que contribuye a prestigiar el sistema democrático y la estabilidad política de cataluña convertir los procesos electorales en consultas plebiscitarias como se encargan de repetir un día sí y al otro también

y cree de verdad que es muy de izquierdas sepultar con esto todos los debates sociales que son los que de verdad preocupan a los catalanes incluso a los que estuvieron sosteniendo la estelada en aquel acto de hace unas semanas

en españa que merecería muchas más reflexiones estoy hablando de un problema de unidad y de cohesión interna que el nacionalismo conservador

y ese problema que por cierto también lo ven aquí otros nacionalistas y que por eso también tienen que reconocer que el proceso soberanista catalán

por ello yo estoy de acuerdo sin que sirva de precedente con el portavoz del gobierno vasco señor erkoreka

en buena parte se trata de un camino que ya ha sido recorrido en euskadi y es verdad le falta añadir ya se lo añado yo que ya hemos visto cuáles han sido los resultados de aquel camino

y ustedes los primeros de ese viaje hacia ninguna parte al que nos llevaron los experimentos soberanistas de la etapa del lehendakari ibarretxe

ha dejado al parecer no muchas añoranzas en este país ni siquiera en su propio partido

parece ser la única fuerza política que añora al señor ibarretxe

al parecer lo que ustedes pretenden es trasladar aquí a euskadi los problemas de acuerdo interno que actualmente parece cataluña y que aquí ya padécimos en un pasado

para conseguir ponernos de acuerdo entre diferentes en defensa de las políticas de bienestar de los ciudadanos vascos y del impulso a la actividad económica que necesita la sociedad vasca

como los que hemos impulsado y los que hemos acabado firmando con el pnv son los que realmente preocupan a la gente y es lo que quiere la gente que se haga

y populistas como las que patrocina la derecha nacionalista con el acompañamiento impagable de esquerra republicana por todo ello nosotros vamos a votar en contra de su propuesta y lógicamente a favor de la enmienda que hemos presentado una enmienda que expresa en primer lugar la preocupación por el desencuentro que se ha abierto entre las instituciones de cataluña y las del estado

por el parlamento de cataluña del denominado derecho a decidir un desencuentro que habrá que superar necesariamente desde el diálogo desde la voluntad de entendimiento y desde el deseo sincero de hacer frente de una manera conjunta a los problemas reales de la ciudadanía la catalana y la del resto de españa

y el resto son aventuras que van a un callejón sin salida muchas gracias eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den egibar jaunak dauka hitza

eta hori da gatazka politikoaren ezaugarria demokratikoki konpondu behar dena porque cuando se habla del estado de las autonomías y la crisis del modelo

subrayamos siempre que esto de que fueran diecisiete autonomías

es una decisión política entre otras cosas para diluir los hechos diferenciales nacionales catalán y vasco y también gallego

diseñar un modelo de convivencia política entre naciones que se reclaman como sujetos políticos cómo conciliar ese esquema de un estado nación que se presenta como una e indivisible

realidad nacional más que la suya propia cómo puede convivir realidades nacionales que también aspiran a tener esquema de estado

resolver por vías democráticas y a través de la profundización democrática porque hombre legalidad legitimidad se puede hablar

pero es evidente que hay un elemental principio democrático que obliga a los gobernantes a atender aquello que libre y democráticamente se exprese por parte de la ciudadanía

porque aquí se está hablando y se está apelando repetidas veces no esto lo deciden todos los españoles

promueva usted una iniciativa a través de su grupo upyd

qué contabilidad le va a valer a usted qué contabilidad va a valer a los vascos nacionalistas

es esa la solución el segundo punto reza textualmente instar al gobierno de españa

con el objetivo de posibilitar la celebración de una consulta de los ciudadanos y ciudadanas de cataluña para decidir libre y democráticamente su futuro una consulta que dicen

pero se dice que sea legal que se posibilite

y democrática expresión de los catalanes de los que piensen de una manera y de otra

entonces nosotros no podemos menos que solidarizarnos de identificarnos

también del pueblo catalán zer gertatzen da

un folio en blanco que es lo que ofrece hoy bildu para que todos podamos escribir

la comisión de autogobierno y vino un texto articulado y el mismo arnaldo otegi decía bueno habíamos pedido concreción pero no tanto entonces los textos que

necesarios en aquel momento tuvieron el recorrido que tuvieron y no son la expresión de un fracaso ahí están ahí están y ya veremos quien utiliza o referencia

en los mismos pero aquí están aprobados por esta cámara y negados por el congreso de los diputados eso sí legalmente orduan

arratsalde on guztioi señor lehendakari señor consejero

me van a permitir que comience con una anécdota personal

de estos que te llaman de vez en cuando para tomarse algo y hablando

y de estas cosas de políticos que a veces parece de las que nos enredamos los que estamos aquí

sí sí que vamos a hablar en el parlamento vasco vamos a aplaudir a respaldar a felicitar a los catalanes por a felicitarles por el lío que tienen montado digo sí sí

el sueldo los vascos a que habléis de cataluña y por eso yo quiero comenzar

mandando un mensaje revolucionario un saludo revolucionario a esos miles de vascos que son cada vez más que están hartos cansados y aburridos del debate identitario de los debates políticos para políticos y que quieren políticos que gestionen sus problemas y sus necesidades

un mensaje revolucionario porque lamentablemente defender estas cosas se está convirtiendo poco más o menos que un acto de revolución

que también el partido nacionalista vasco a través de usted nos ha anunciado que no se quieren hacer daño en ese camino a la independencia con estos señores la realidad

es que la sociedad catalana como cualquier otra sociedad como cualquier otro lugar del mundo en el que hay cotas de desarrollo

económico y cívico notable que ha alcanzado un nivel de bienestar notable merece ser felicitada cómo no por muchas cosas

de actitudes y de manifestaciones políticamente correctas merece ser compadecida también por otras cosas porque la sociedad catalana

felicitada pero también ser compadecida merece ser felicitada

por su pujanza por su tradición y por su iniciativa empresarial

inequívocamente vinculada con el entendimiento por su historia de colaboración por ser una tierra magnífica por haber dado personajes ilustres

una tierra de acogida pero merece ser también compadecida

irresponsables e interesados que han llevado a la política catalana a una situación de confrontación en espiral inédita en su historia poco más o menos le han llevado a la sociedad catalana a través de la política a un callejón sin salida

por tener unos dirigentes políticos que al amparo de los gritos más variados y variopintos

que no se hable de sugestión económica de los gastos superfluos del derroche de la utilización de fondos públicos para crear una malla de clientelismo

de la importante corrupción que también a ellos les afecta han logrado sus políticos que no se hable de qué es lo que han hecho con el poder que han ostentado y que ostentan de cómo responden al mandato ciudadano de resolver problemas en lugar de crearlos por eso también la sociedad catalana debe de ser compadecida

la triste realidad es que la política catalana ha pasado de estar guiada por la mesura y el espíritu de entendimiento

que tiene una foto fija en el año mil novecientos noventa y dos sin ir más lejos ha pasado a la radicalización de las diferencias a través del debate identitario

la triste realidad es que la política ha contaminado la calle y ha utilizado para ello

definió como perversión del lenguaje de esta suerte

derecho a decidir ha pasado a convertirse en un tótem democrático en una línea que separa a los que creen en la democracia de los que no

se negaría a que los ciudadanos decidan su futuro qué demócrata en su sano juicio puede negarse a esta frase

se marca el terreno de juego poríferamente se define terminológicamente

y se impide el debate objetivo jugada redonda el que está a favor del derecho a decidir es un demócrata y el que no está a favor de tragar con esos eufemismos no es un demócrata pero la realidad también

insulto es un insulto para los ciudadanos catalanes afirmar que no tienen derecho a decidir es un insulto y es una mentira es un insulto porque presupone que los ciudadanos de cataluña igual que los vascos son poco más o menos que ovejas

al menos toda la democracia es un insulto decirles que no tienen y no han tenido derecho a decidir y es una mentira porque es

el verdadero objetivo de los nacionalistas que es la asociación la independencia la ruptura el aislamiento

incluso un eufemismo cobarde y los políticos no somos meros catalizadores de ninguna inercia histórica

estamos absolutamente convencidos que los políticos somos

de una herramienta ideada para gestionar diferencias y ordenar la convivencia cuando se altera la convivencia y se agranda las diferencias la solución

no es abundar en el enfrentamiento la solución no es una huída hacia delante la solución pasa primero por decir la verdad y asumir responsabilidades la responsabilidad en primer lugar de quien tienen la obligación de buscar el entendimiento y el progreso

y no con las tripas la responsabilidad de alentar a las masas para que emprendan un camino de incertidumbre y de choque de enfrentamiento aquí no ha fallado la herramienta de convivencia aquí no fallan las herramientas de las que nos hemos dotada para convivir no ha fallado el modelo ideado para convivir han fallado quienes tienen la responsabilidad de gestionar

y de eso señorías no se habla no se pone el dedo en la llaga no estamos hablando ni del fracaso de la sociedad catalana

estamos hablando del fracaso de los políticos catalanes

la democracia no es solo votar cada cuatro años la democracia no es solo manifestarse

la democracia no son solo derechos ni obligaciones la democracia también es cumplir con la ley con las normas

que no están al albur de políticos circunstanciales ni están al albur de intereses particulares

es que ni por historia ni por identidad ni por amparo legal los catalanes se merecen esta deriva hacia la nada en la que les han embarcado los políticos

es que el mundo se ha transformado de tal manera que las recetas del pasado los eslogans incluso las ideologías que antes dieron respuesta a los problemas hoy se han quedado viejas no estamos en una época de cambio

de época y el pasado por mucho que algunos les pese no es el futuro y mientras el mundo experimenta una búsqueda permanente de sinergias en españa hay quienes se empeñan en rebuscar en lo que nos diferencia

ceden continuamente aspectos de su soberanía para unirse y competir mejor en un mundo cada vez

hay quienes aquí defienden sacar a cataluña y euskadi de ese camino de apertura y sumirnos

de imprevisibles consecuencias pero seguro que ninguna de ellas positiva y mientras el mundo civilizado busca cómo ser un lugar mejor aquí hay quienes buscan cómo ser

presidenta cataluña igual que euskadi pero cataluña merece ser felicitada por muchos motivos sin duda pero los catalanes hoy

viven en una sociedad más tensionada y objetivamente más enfrentada

muchas banderas sin duda donde se calculan y se pesan identidades sin duda

donde se ha hurtado al ciudadano el principal derecho que le asiste que no es ese eufemístico derecho a decidir

donde se le ha hurtado el derecho a vivir tranquilo y ese derecho se les ha hurtado y eso lamentablemente

a nosotros y a nosotras como país no nos gustaría ser como ustedes como partido político nos interesaría hacer este debate con grupos políticos que tengan discurso propio como expresión de un pensamiento propio también nos da la sensación de que ustedes tienen la autonomía

y en ese caso cuando queramos hacer ese debate por favor pásenos el teléfono

de madrid porque está claro que y sino pregúntenselo a sánchez camacho

qué tipo de autonomía tienen que a la primera de cambio desde madrid

se desmarcan un poquito del discurso oficial del partido en españa por otro lado usted ha mencionado señor pastor

presidente del partido socialista de euskadi mis respetos al mismo y por otro lado quisiera decirles que si todo el partido

lo que el señor egiguren dice es decir si el partido socialista de euskadi

de una constitución vasca para los siete territorios de euskal herria ahora mismo haríamos más fácilmente seguramente todos los acuerdos necesarios con ustedes

sí gracias presidenta aunque efectivamente el grupo proponente no ha replicado absolutamente nada al resto de grupos

es un tema importante como para tomárnoslo todos muy en serio

en fin espero que el gobierno de españa y los grandes partidos políticos españoles estén a la altura de lo que se pretende

cataluña en concreto desde el gobierno nacionalista de cataluña quiero decir que nosotros obviamente vamos a votar nuestra enmienda que creo que es muy clara

y respetar la legalidad vigente el ordenamiento jurídico y la constitución española como garantía de nuestra convivencia democrática y de nuestros derechos ciudadanos quien pretenda cambiarla tendrá que ir al congreso de los diputados y lograr la mayoría impulsar los cambios que considere nosotros evidentemente lo hemos hecho para defender algunas cuestiones que consideramos que son de interés el partido nacionalista vasco

y también amaiur no apoyaremos la enmienda socialista

su preocupación por la situación de cataluña situación de la que por cierto también es responsable muy responsable

partido socialista por las políticas impulsadas en los últimos años en relación al estatut y todo lo que ha rodeado la política en cataluña es muy responsable el partido socialista

ocurriendo y del envite que tenemos encima de la mesa

de la transaccional firmada por eh bildu y el partido nacionalista vasco que creo que ya he definido

porque pretende reconocer una vía que insisto es antidemocrática la vía que se pretende desde el gobierno de cataluña es una vía antidemocrática que no respeta o pretende no respetar la legalidad vigente y que pretende además sustentar

detrás de ella otras muchas mentiras e insisto el derecho a decidir el derecho de autodeterminación es una falacia no existe es una mentira el que ustedes defienden porque efectivamente los ciudadanos llevamos decidiendo desde el inicio

catalanes y los ciudadanos vascos pero el derecho a decidir que ustedes proponen el derecho de autodeterminación es una falacia es una gran mentira no existe ese derecho

y la soberanía reside en el conjunto de los ciudadanos españoles que forman parte del estado por lo tanto la soberanía reside en el conjunto de los ciudadanos españoles que somos los que debemos decidir entre todos sobre la estructura

propone efectivamente que cataluña y el gobierno de españa

es decirle al gobierno de cataluña que no que lo que sepretende es imposible es irrealizable porque su vía

diálogo que puede haber en torno a esta cuestión entre el gobierno de españa y el gobierno de cataluña tiene que decirle que no es un imposible y lo que tiene que hacer el gobierno de españa es aplicar la ley cada uno de los artículos de la constitución española en lugar de mirar para otro lado en lugar de disimular en lugar de dar largas tiene que decirle al gobierno de cataluña que esto es imposible

cada uno de sus artículos cada uno de los artículos de la constitución española para parar este disparate antidemocrático que pretende romper

esto es lo que tiene que decir el gobierno de españa no creo que este sea un debate de políticos para políticos yo creo que es más bien un debate de nacionalistas para nacionalistas

romper la convivencia y tapar de paso efectivamente sus vergüenzas casos de corrupción crisis económica recortes sociales y paro

tenemos que desmontar todo este cúmulo de mentiras acumuladas durante demasiados años cúmulo de mentiras acumuladas por los diferentes nacionalismos que existen en españa acumuladas durante largos años

que mienten y que es falso que no existe el derecho a la autodeterminación y que el futuro del país lo vamos a decidir entre todos y por lo tanto ahí no hay margen de diálogo salvo el diálogo que consiste en decirle que no que esa vía es inconstitucional y por lo tanto es un fraude en fin y termino mostrando mi solidaridad

víctimas durante los últimos años especialmente víctimas de políticos corruptos y de políticos irresponsables este es el discurso de upyd que defendemos aquí y en cualquier parte de españa porque creemos firmemente en él gracias

diciendo que el estado español está en crisis y es cierto

que se cuestiona el sistema político español y es cierto que la arquitectura institucional de españa está en cuestión y es cierto y nosotros queremos repensar

porque pensamos realmente que las disfunciones que se puedan haber dado que las hay hay que hacerlas entre todos y no jugando un poco al sálvese quien pueda

es un debate falso y que no se ajusta a la realidad claro que hay problemas

en las autonomías en la arquitectura institucional en la crisis de la política

una solución porque sino no tendrá solución por mucho que ustedes o los catalanes se empeñen en crear una realidad alternativa que no tiene salida posible si no es desde el acuerdo desde el consenso y desde el trabajo conjunto porque es verdad que puede haber frustraciones en la sociedad catalana

que las campañas anticatalanas de muchos dirigentes del pp provocaron desafección respecto de españa o no han oído ustedes en la cadena humana

eso es un problema emocional de desafección provocado por muchos errores de planteamiento y nosotros tendremos nuestra culpa y otros tendrán más

y metiendo a la sociedad catalana en una dinámica de una solución sin salida posible porque no se puede salir de una situación como esa haciendo las cosas con las tripas

y usando además esa literatura fantástica del derecho a decidir para tapar los errores de gestión que de forma evidente se están dando en cataluña y que se intenta y eso es evidente que no se hable de ellos por parte

nos habla de la cafeína y del café para todos en cualquier caso concluirá usted

porque no parece que sea comparable la realidad del autogobierno vasco con la de extremadura o con la de murcia o con la de castilla león no se puede hacer ese símil que usted hace ni se puede mezclar esa especie de falsa dicotomía entre legalidad y legitimidad porque entonces es cuando entramos en un terreno peligroso

deben ir siempre de la mano porque sino poner la legitimidad o esa supuesta legitimidad por encima de la legalidad nos lleva a soluciones muy poco democráticas creo que usted lo sabe

los textos del camino que recorrió el señor ibarretxe están aquí y están aquí para qué señor egibar qué se va a hacer con esos textos que nos llevaron donde nos llevaron

hablar de que eso va a ser exactamente lo que va a poner en marcha este gobierno de lo cual me congratulo pero me gustaría saberlo si no es así si el camino es otro

sin pegarnos mucho a ver si entre los dos podemos recorrer un camino que de paso igual nos joroba a todos los demás por cierto señor egibar igual usted también

que en esta cámara por mucho que ahora ustedes tengan la mayoría hay otra mucha gente que no coincide con sus planteamientos

no lo somos y por lo tanto somos parte de un proyecto común del que estamos tremendamente orgullosos que se llama partido socialista obrero español y que en gran parte nació aquí

importante de este proyecto y por lo tanto no nos haga usted trampas

nos llamamos mutuamente muchas veces y nos décimos lo que nos parece

sentido común mucha responsabilidad de país porque algunos se les llena la boca de hablar del país

como se ha hecho una propuesta también de eh bildu sobre los textos de egiguren

pero para que tengamos clara la cuestión por si el entendimiento va

en segundo lugar los textos aprobados en esta cámara están en esta cámara el depositario

han sido nuevos parlamentarios también pueden exactamente revisar debates y ver exactamente que es lo que se aprobó no vinculan a nadie no vinculan a nadie

por ejemplo ustedes estuvieron cerca de unos denominados papeles o acuerdos de loyola pueden servir también ahora no me digan aquello de que han prescrito

genérica de lo que divide lo que une lo que incluye lo que excluye la búsqueda de consenso y

al tema de acuerdo entre diferentes hay algún acuerdo que no sea entre diferentes

no parece que haya especial mérito el acuerdo siempre es entre diferentes

en que entre los diferentes en esa relación siempre hay uno que siendo diferente tiene derecho a veto y normalmente ese diferente no solamente tiene el aval de la legalidad vigente

esa mayoría absolutamente insuperable para una realidad política como la nuestra que refrenda su posición porque

tenía toda la legitimidad democrática cuando se hace un acuerdo cruzado siempre que esté de acuerdo el unionista o el constitucionalista va delante el problema es

y el constitucionalista no esté de acuerdo porque reclama su condición de diferente porque también tiene derecho a veto ese es el problema

porque los acuerdos entre diferentes siempre lo son entre diferentes serán más iguales más próximos

no estamos todos en un único partido político horregatik y hablando e intercalando lo que ha dicho el partido popular porque me han dicho que ha comido solo ese amigo imaginario no sé dónde está pero a ver en los procesos políticos

nos decía un compañero de partido hay catalizadores

y los procesos que catalizan catalizan y en este caso refiriéndome a cataluña es evidente que ha habido

muchísimas cosas decía ahora el señor pastor en referencia a la gente que no se siente querida decía que era exclusivamente un problema emocional no no pero es que aquí hay un estatuto aprobado un candidato

que dice que va a respetar y hacer respetar lo que el parlamento por mayoría decida lo que ocurre es que después sorpresivamente

y se olvida y después viene el famoso estatut

arotza carpintero ebanista trocear el estatuto se niega el pacto fiscal no hay una solución para cataluña y en este momento el estado es que aun queriendo no tiene solución no tiene solución

a realidades nacionales como la vasca y la catalana entre otras se les mezcla

nuevamente y no estamos hablando de los tiempos de viriato no estamos hablando del golpe

que es fallido el militar pero desde luego tiene un objetivo político

hay una situación a la que el estado le tiene que dar solución y puede aprovechar perfectamente la crisis de modelo que tiene para efectivamente a esas realidades nacionales

se arbitre un sistema y un modelo de convivencia ese es el deseo y los textos no son sagrados pero están está el discurso de aquí están las participaciones de unos y otros están también los discursos de madrid

está el discurso del señor rubalcaba en respuesta a la presentación

está la respuesta del propio rajoy sobre todo eso se puede hablar pero a cataluña que está siguiendo un proceso impecablemente democrático todos nuestros respetos

como dice el propio himno del segadors

es evidente que como no se permita avanzar desde luego ese golpe de hoz democráticamente va a ser todavía más contundente en cataluña

por encima de elementos catalizadores porque elementos catalizadores hay en una dirección y en otra señor egibar

pero anda que no hay fábrica también de lo contrario anda que no hemos tenido que soportar también mensajes que son

difícilmente digeribles por parte de nacionalistas muy sectarios en cataluña y también aquí en euskadi anda que no hay elementos catalizadores de una y de otra pero de lo que se trata es de

de lo que se trata es de no tensar más la situación de lo que se trata es de utilizar las herramientas de las que nos han dotado los ciudadanos

por lo menos para gestionar bien la ley y el sistema para que sus vidas puedan ser razonables y no estén permanentemente tensionadas por los políticos y eso es lo que está sucediendo en cataluña alguien es capaz de defender que la cataluña de hoy es mejor que la del año mil novecientos noventa y dos por ejemplo

ha sido el problema quién se ha vuelto loco aquí políticamente hablando

a una buena parte de la sociedad que no estaba en esa clave por qué con qué objetivo esto es un movimiento

es un sagrado movimiento nacional que mientras se defiende te permite no tener que hablar de las cosas cotidianas aquellas por las que la gente te paga y para las que te han elegido

que tiene cataluña son única y exclusivamente responsabilidad de los políticos catalanes no de nadie de fuera no hay un enemigo que quiere cargarse cataluña

de perjudicar a ningún catalán son la torpeza la incapacidad

mayoritariamente a lo largo de su historia democrática nacionalistas los que han permitido que hoy cataluña esté en la situación en la que está y decir lo contrario es faltar a la verdad

vamos a empezar a desmontar mitos porque los nacionalistas ustedes en este caso junto con bildu al alimón explotan un sentimiento identitario

a nuestro juicio de una manera irresponsable porque ya se lo he dicho en alguna ocasión la identidad es imposible de homogenizar porque hay tantas como ciudadanos existen

que les da la legitimidad o la dispensa para dos cosas les da una dispensa ideológica

que les permite actuar al margen de la ley es decir los marcos jurídicos de los que nos hemos dotado

porque como nuestra identidad como nuestro sentimiento nos lo permite ningún marco es bastante

de nuestros intereses les da esa dispensa ideológica y les da una dispensa política también porque les permite

no hablar de la verdad y cuál es la realidad la realidad y no lo dice el partido popular la realidad es que la independencia de cataluña como la independencia de euskadi en las que ustedes están embarcados con bildu y el señor lehendakari nos ha fijado en el año dos mil veinte es verdad que antes nos lo había fijado en el dos mil quince veremos si

pero esa independencia a la que ustedes nos abocan nos lleva

nos lleva fuera de europa nos lleva a la incertidumbre porque no sabemos que va a ser de euskadi de una euskadi hipotéticamente independiente nos lleva al empobrecimiento el señor jaime malet que no es sospechoso de ser

dice que hay una preocupación muy grande entre las empresas radicadas en cataluña de carácter

las multinacionales y dice que podría llevar este proceso a una masiva deslocalización de puestos de trabajo y de inversión a una progresiva

segura inestabilidad política y económica como la que se prevé en los próximos años no favorece a cataluña y tampoco favorece a euskadi es un empobrecimiento

de la calidad de vida de los ciudadanos y sobre todo nos lleva a un tensionamiento insoportable no podemos volver a tener una sociedad y una política vasca tensionada como a la que nos llevaron ustedes

no nos pueden poner el modelo actual catalán político como un espejo o como una referencia es inaceptable que pretendan vendernos como algo positivo

es inaceptable eso es lo que ustedes quieren para euskadi

cuando el mundo mira al futuro cuando el siglo veintiuno está ya aquí y tenemos que amoldarnos cuando nuestras empresas tienen que competir en un mundo cada vez más complicado

aquí nos vamos a encerrar más ese es el modelo del partido nacionalista vasco con el de bildu

nos salimos de europa porque nuestra identidad nos lo permite

paradójicamente hablando y termino señora presidenta con una referencia que seguro que le gusta señor egibar porque hablaban del proceso constituyente

llega hoy ese derecho de los territorios forales o del ámbito vasco de poner en vigor nuevamente y vivir su propia autonomía en toda la plenitud posible siempre que no choque con aquellas facultades soberanas del estado absolutamente indispensables para regir esa colectividad de pueblos en solidaridad que forma el estado y que forma españa nosotros hicimos taxativa en la que reconocíamos los poderes esenciales del estado que debe ostentarlo soberanamente solo el estado lo digo para evitar equívocos

de toda esta larga negociación se han producido y la última cita no menos interesante que quede bien claro en el reconocimiento de los derechos históricos no había ni intención autodeterminatoria ni quitar el techo constitucional ni salirnos de la constitución

hoy ustedes van hacia atrás no en el tiempo el tiempo pasa pero ustedes retroceden y lo peor de todo